presidenta señorías buenos días a todos en primer lugar agradecer a la mesa en aceptar la urgencia de esta

iniciativa que hace referencia a las graves inundaciones que están afectando al territorio de álava especialmente como consecuencia de desbordamientos de ríos y arroyos así como desprendimientos de tierra en diversas zonas del territorio histórico de álava y si considerábamos urgente

la situación se ha complicado más si cabe

y la semana del veinte al veintiséis de enero y el consiguiente deshielo posterior han provocado inundaciones en diversas zonas

infraestructuras la mayoría de estas afecciones han sido en fincas y caminos rurales y como les decía esas lluvias y nevadas han vuelto en estos últimos días

que cuando presentamos la iniciativa en lo que se refiere a caminos las principales incidencias son por anegación de fincas y infraestructuras y especificando por zonas principalmente las que se encuentran en el ámbito de la zona de desembalse de la presa de ullíbarri gamboa

en las cuales se ha hecho una valoración aproximada de los daños por encontrarse todavía anegadas y ahora

aún más complicado otra de las zonas afectadas por este motivo y que se ha visto seriamente

asimismo y también en el término municipal de vitoria y arrazua ubarrundia se han producido desbordamiento de arroyos y ríos de menor cantidad que el zadorra pero que han ocasionado varios desperfectos

ocasionando fuertes desprendimientos de taludes que entrañan grave peligro principalmente en caminos rurales

consecuencia de su escorrentía por zonas de elevada pendiente se han producido daños en caminos rurales en diversas zonas del territorio histórico

alaveses podemos decir que las entidades afectadas

al encontrarse la tierra colmatada de agua probablemente las incidencias hayan aumentado la valoración

con el fin de devolver a la normalidad dichas infraestructuras y ser utilizadas plenamente el presupuesto inicial estimado ronda un millón ochocientos mil euros todo ello pendiente de una valoración final

una completa exploración de todas las zonas afectadas nos encontramos ante caminos y accesos que en unos casos están impracticables y permanecen cerrados

a la inmediata reparación de los daños con carácter de urgencia porque entraña un serio peligro para los usuarios e impide el acceso de agricultores y ganaderos usuarios de estos caminos

en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan las labores propias

no se puede demorar en el tiempo o de lo contrario dan al traste con la campaña

otros de estos caminos aun estando afectados pueden demorarse en su reparación porque el acceso es factible con precaución o porque su uso

habitual los daños de las inundaciones datos del viernes nueve de febrero han afectado también a más de trescientos hectáreas de cultivo y ha implantado sobre todo cereal

se ha perdido ya en unos casos por arrastre de la capa fértil y con ello la semilla fertilizantes

y está cubierta de agua y en estos momentos es difícil valorar su afección

al permanecer tanto tiempo la zona anegada se ha provocado asfixia radicular por lo que se ha perdido la siembra por completo en definitiva que nos encontramos ante serios problemas especialmente para el sector agrícola

como en daños en los cultivos el número de explotaciones agrarias afectadas

datos provisionales como les decía pendientes de valorar en cuanto a la climatología y los cauces vuelvan a la normalidad explotaciones que por otra parte no es la primera vez que pasan por esta situación

como decía explotaciones que en situación de lluvias intensas y desembalse de la presa pasan sí

y que entendemos desde el grupo popular importantísimo que con carácter de urgente se priorice la ejecución de las obras necesarias para evitar

además desde esta cámara como aprobamos la ley de política agraria alimentaria de euskadi concretamente el veintitrés de diciembre de dos mil ocho nos comprometimos esta cámara y el gobierno a desarrollar mecanismos para dar solución a situaciones como la que hoy nos ocupa y esta ley

artículo ochenta y tres establece los mecanismos para la declaración de zona catastrófica para aquellas zonas que han sufrido daños y pérdidas sustancialmente importantes en las producciones agrícolas ganaderas o forestales

eventos imprevisibles la administración general de la comunidad autónoma del país vasco competente podrá articular un conjunto de medidas que sean adecuadas a la situación creada y contribuyan al restablecimiento de la normalidad agraria en las zonas

la financiación de los gastos que se deriven de la reparación de los daños catastróficos producidos y luego el artículo ochenta y cuatro que forma parte de este

de daños catastróficos fondo de catástrofe dice

las administraciones públicas vascas crearán un fondo de catástrofes con las dotaciones presupuestarias que las mismas acuerden

articularán los cauces necesarios para la concesión de créditos

orgánica funcional y económica correspondiente reglamentariamente se establecerá el sistema de gestión del fondo

no se ha hecho ya lo habíamos solicitado anteriormente hay que recordar en el año dos mil diez con motivo de las inundaciones que afectaron de manera importante a gipuzkoa

ni mostró ningún interés dejó a otras administraciones

el punto tercero de nuestra enmienda insta al gobierno vasco a que junto con las administraciones competentes elabore una planificación urgente de las actuaciones necesarias para evitar los

a su paso por álava arroyos y ríos del territorio alavés donde periódicamente se producen inundaciones esta es la iniciativa que hemos presentado el grupo popular

algunos grupos han presentado enmiendas enmiendas en general en positivo a las que hemos tenido oportunidad de hablar con los portavoces

nos ha servido para intercambiar impresiones y concretar algunos aspectos de estos hechos

firmar una enmienda de transacción a la que hemos tenido

y lo siento de verdad porque el lunes en juntas generales de álava se debatía este tema se llegó a una enmienda de todos los grupos de la cámara de juntas juntas generales de álava territorio donde las afecciones de las inundaciones son muy importantes la verdad es que

encontrado receptividad por parte del portavoz del grupo socialista

prioritarias que son necesarias en este momento como es el desarrollo de la ley

por lo menos se aprobó con la voluntad de solucionar un problema reiterado el grupo socialista presenta un cuarto punto en su enmienda donde dice

el proyecto constructivo y posterior licitación de las obras de actuación en el paso

que sirve de enlace con la autovía vitoria gasteiz en dirección bilbao para evitar las graves afecciones etcétera etcétera insta también

al ayuntamiento de vitoria al gobierno foral de álava

considera imprescindible tener ahora en cuenta pues el lunes no tenía en cuenta y qué casualidad que esta mañana

y su portavoz en juntas generales de álava en esos espacios pagados por el partido socialista para hacer su publicidad decía que estaban encantados porque en las juntas habían llegado a un acuerdo

distintos aspectos que va recogido en la enmienda de transacción y no hacía referencia a este aspecto tan importante quiero pensar que el portavoz en este caso señor prieto y la portavoz de juntas generales de álava del partido socialista tienen comunicación

por la coherencia sobre todo es una pena señor prieto yo sé que

si realmente el interés está en dar una solución a los problemas que tenemos en álava o su interés es otro yo creo que

insta al medio ambiente a la confederación hidrográfica

durante el año dos mil nueve y dos mil once gobernando en el ministerio

en el gobierno vasco ayuntamiento de vitoria formaban parte del apoyo al gobierno en la diputación tenían la conjunción planetaria perfecta para haber hecho este proyecto entonces no era interesante este proyecto no era prioritario es hoy hoy catorce de febrero porque

no era prioritario para el partido socialista esto me invita a pensar que su interés no sé si es resolver el problema de las inundaciones en álava porque no lo entiendo igual tiene una explicación que ayer no me la dio y yo la voy a esperar hoy

señora presidenta señoras y señores señora ocariz

ha dedicado usted demasiado tiempo a hablar de mí

partido de otros lugares y nada absolutamente nada a hablar de las inundaciones y parecía que su iniciativa tenía una cierta nobleza

de nobleza que la que ha planteado en su intervención porque efectivamente y a iniciativa del partido socialista en las juntas generales de álava

a la catástrofe producida como consecuencia de las recientes lluvias nevadas inundaciones etcétera y

se pudo producir un acuerdo entre todos para en el ámbito de las juntas generales

aquellas cosas que les corresponde a ellos en primer lugar decidieron que había que

planteaban que hubiera recursos suficientes que se desarrollara el reglamento de la ley

a todo esto se planteaban también determinadas obras necesarias de urgencia para evitar las inundaciones

con los agentes afectados en todo este problema de las inundaciones

que se ha aprobado en las juntas generales de álava se vuelve a traer aquí y se trae aquí supongo que para que esta cámara no haga una fotocopia literal o incluso

lo que ha sido el pronunciamiento de las juntas generales de álava sino para que en todo caso se le aporte un valor añadido se haga algo más por parte de esta cámara que cacarear a la baja lo que ya se ha aprobado en otra institución porque fíjese yo me siento tan representado y tan coordinado

que no necesito venir aquí ha repetir lo mismo para darle validez a lo que ya se ha decidido en esa cámara con el pronunciamiento de las juntas generales para repetirlo aquí a la baja me sobran las juntas generales

a consumir tiempo porque quiero recordarle que usted empieza entre otras cosas porque plantea una proposición no de ley en la que empieza diciendo que

y ahora ya en la transaccional acudiendo a lo que estaba planteando el partido nacionalista vasco

dice que se analice con urgencia la posibilidad

no estamos de acuerdo con su grupo no estamos de acuerdo con el grupo nacionalista y no estamos de acuerdo con

lo que se ha decidido en las juntas generales y que en vez de proponer a este parlamento que declare que pida al gobierno declarar

pero es que además en esta cámara la razón debiera de llevar no a acudir como bomberos ante un problema de inundaciones

a intentar evitar estos problemas y el pasado será el que haya sido pero nosotros no renunciamos como usted renuncia al presente y al futuro y por lo tanto

se repite de forma crónica un problema de inundaciones en vitoria y también en algunos otros municipios cercanos

que es un problema endémico este que es un problema que no se ha resuelto aunque se han ido aplicando distintas medidas es el momento ahora sí es el momento porque la vida

porque no vamos a detener el mundo ahora es el momento que no se ha hecho antes no se ha hecho antes pero ahora sí es el momento de hacerlo y por eso estamos planteando que ahora se haga claro que sí

porque entre otras cosas este problema de las inundaciones no depende de ninguna decisión política

y es cómo vayan las inclemencias del tiempo y que daños causen y por lo tanto el papel de la política es intentar resolver que esas inundaciones no se vuelvan

hay que actuar en el río batan en el río zapardiel para eso hay que actuar

para eso hay que actuar en un puente que estrecha el cauce del río

no solo a vitoria sino también al municipio de iruña de oca para eso hay que actuar en el puente entre abechuco e yurre y entre abechuco y gamarra mayor para eso hay que actuar en un montón de sitios

hay que proteger las riveras hay que ensanchar los cauces hay que hacer algunas infraestructuras hay que hacer un montón de cosas y para eso hace falta el concurso del ayuntamiento de vitoria

del ministerio de medio ambiente y también de la confederación hidrográfica del ebro porque todos ellos tienen competencias y presupuesto para atender y resolver todo esto y no se está haciendo

demos un paso más si de verdad está tan preocupada por las inundaciones no ponga el foco en el partido socialista

en la mayor parte de su intervención aquí sino en el problema de fondo que tienen los ciudadanos

y el problema de fondo es que no estén mirando al cielo a ver qué va a pasar con lo suyo porque no hay ninguna forma de defenderse

el último lo hemos tenido hace apenas cuatro años antes teníamos otros se han hecho cosas para desviar el problema

se han hecho las obras suficientes ni se han tomado las decisiones suficientes para resolver el problema

y de hecho el año pasado ya se hizo un convenio entre el gobierno vasco y el ayuntamiento de vitoria se hizo un convenio con la agencia y se hizo un convenio para que en un plazo de siete años porque se veía esa necesidad se hicieran cosas que afectan a las competencias del gobierno vasco y que afectan también a las competencias del ayuntamiento de vitoria pero no es suficiente hace falta más

otros agentes y porque en obras que afectan a las infraestructuras de comunicación de este territorio tiene que intervenir también la diputación foral de álava y usted lo que no quiere es compromisos usted lo que no quiere es llevar un pasito más adelante las cosas y como le digo encima ha tenido poca solidaridad con las juntas generales con su grupo juntero con su gobierno foral que cuando ellos se pronuncian a favor de que se declare

usted dice aquí vamos a estudiarlo usted rebaje el tono

y no enrede en el partido socialista que no hace falta para nada pronúnciese sobre las inundaciones pronúnciese sobre cómo resolver el problema de las inundaciones

y por eso en nuestra propuesta estamos de acuerdo con todo el que esté de acuerdo en esta cámara con todo el que esté de acuerdo en esta cámara no con otra cosa en que este parlamento inste al gobierno vasco a declarar zona catastrófica nos pronunciamos para declarar zona catastrófica no para ir a la universidad a estudiar

para declarar zona catastrófica y estamos de acuerdo con todo el que quiera eso estamos de acuerdo con todo el que plantee

para dotarlo de recursos y para atender que por cierto aún sin reglamento ya ha atendido inundaciones en este periodo anterior ya ha atendido sí

ha atendido sin reglamento a inundaciones y además estamos de acuerdo con que todos los que están afectados y concernidos en este asunto se junten pero también estamos de acuerdo

y no se escondan en declaraciones vacías de contenido

hace con apoyo de upyd y con apoyo del partido nacionalista vasco para que no se resuelva el problema de fondo que son las inundaciones si quieren política de verdad y con mayúsculas tienen la mano tendida del partido socialista y si lo que quieren es entretener y pasar el rato

es mi primera intervención ante un pleno y ante el orgullo de hacerlo se confronta a pesar de mi prolecita edad y supuesta experiencia una tensión nerviosa que

hablar de catástrofes pero no puedo elegir en la temática del estreno

de una manera amplia el texto tanto con la proponente como con otros grupos un poco de racionalibilidad otro de sentido común

alguna gota de san valentín puede que haya ayudado a lograr el acuerdo

tiene una lógica ante la situación generada por unas circunstancias

esperando a que el gobierno vasco que en general se le echa la culpa de casi todo quede eximido de la meteorología más o menos adversa

son un negociado ajeno este pacto parece que de momento no ha provocado una tempestad pero ya esta mañana algún chaparrón ha caído efectivamente las lluvias y las nevadas de los días de enero

dejaron una huella a su paso por algunas zonas de araba provocando daños de grosor en cultivos caminos e infraestructuras constatado los hechos

presentada solicitaba con buena lógica la declaración urgente como zona catastrófica de las comarcas afectadas a partir de ahí acudimos a la ley

esta posibilidad bien porque lo toma la decisión el departamento competente o bien la propuesta de la diputación foral que es lo que ocurrió con salida del cuatro de febrero cuatro días después de que se presentara esta proposición

la diputación foral de araba se dirigió al gobierno y solicitó la declaración de zona catastrófica remitió un informe y evaluaba supuestamente

porque solo cuando se sabe la dimensión del daño provocado se puede estimar la amplitud de la catástrofe o del desastre o de lo que sea que se haya producido

conozco que se ha efectuado algún informe posterior más completo pero el que hasta el momento tiene el gobierno y el que motivó la solicitud de la declaración de zona catastrófica no es muy completo

algunas fincas describe brevemente afectaciones a caminos y pistas sin más datos parciales

doscientos sesenta y nueve mil ciento setenta y cinco euros

añade el último informe que envían como coletilla que se siguen recibiendo llamadas de afectaciones de otros lugares y que esos daños pueden ser elevados gutxi gorabehera a quinientos mil euros redondos y que por tanto el monto total del coste

pues eso que pasaron dos mil sitios primero uno luego otro y luego unos mil insisto creo que el informe se ha mejorado

y claro no es muy contundente para poder hacer eso por un lado

cuándo se aplica el protocolo previsto en la ley a partir de ahí yo lo primero que acudo es al diccionario y el diccionario dice catástrofe suceso infausto que altera gravemente el orden de las cosas nada catástrofes serían cantidad de cosas que nos ocurren cada día voy a la ley

sufrido daños y pérdidas sustancialmente importantes en las producciones agrícolas ganaderas y forestales qué es sustancialmente importante

la ley puso la doctrina el compromiso de la administración y particularmente del gobierno para actuar en caso de perjuicio a la agricultura y ganadería por daños provocados por meteorología pestes y epidemias creo que pone pero la doctrina necesita un manual un catecismo y ese

es obvio que una tormenta puntual y local por ejemplo que ahoga unos tomates cherry

pues no es una catástrofe puede ser una catástrofe para

necesita un mes de psicólogo pero no es una catástrofe en el sentido administrativo de las cosas debemos poner límites para cuando lo es la propia ley

cuando estos sean generalizados prevé en el artículo ochenta y tres la creación de un fondo de catástrofes

para la declaración inmediatamente después en el artículo ochenta y cuatro

pues bien a día de hoy y pasados más de cuatro años desde la aprobación de la ley no se ha reglamentado el fondo lo acontecido así como el informe enviado por la diputación de álava revelan la necesidad de abordar con seriedad

regulación que debería puntualizar el modo de efectuar la evaluación del daño las administraciones responsables de tales tareas del contraste

por ejemplo la propia ley dice que los beneficiarios podrán ser aquellos que tengan riesgos que no estén incluidos en los planes de seguros agrarios

volvemos a la ley en el artículo ochenta y uno dice que hay que desarrollar los planes de seguros agrarios

no está desarrollado tampoco también dice la ley que los agricultores beneficiarios tienen que ser agricultores a título principal

si no sabemos el costo real de afectación a los supuestos previstos en la ley tampoco se dice nada en la ley de pistas y caminos rurales que es el mayor daño que se ha provocado no quiere decir esto que no puedan incluirse en su momento en el reglamento pero insisto en la ley no aparecen como daños auxiliales tampoco se dice

de daño que hay que subvencionar o auspiciar o el método si es por

de bancos si es por subvención directa la ley cita que las administraciones públicas vascas crearán un fondo de catástrofes con dotaciones presupuestarias cuánto ponen las diputaciones cuánto va a poner el gobierno es decir hay demasiadas incógnitas sobre la declaración de catástrofe

luego se han añadido dos puntos muy interesantes sobre la necesidad de abordar la prevención sobre que la gente que tiene que trabajar para que los lugares en los que tradicionalmente hay rebosamientos del agua

entre administraciones y lo único que estamos pidiendo es que prioricen en la medida que puedan

el gobierno vasco en dos mil ocho al hacer la ley de política agraria alimentaria del país vasco efectuó

de estas actividades en euskadi eso sí lo hizo con el sentido de un marco legal amplio que después debía desarrollarse se ve que en algunos temas no se hizo

entiendo que lo razonable para que no quede en papel mojado muchos avances de la misma se requiere un esfuerzo que aborde aquellos aspectos normados y no reglamentados para que la legislación se pueda aplicar con rigor no olvidemos que la ley

dice el consejo de gobierno en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley aprobará las disposiciones en aplicación y desarrollo contempladas en la misma y esta norma

es independiente de si el gobierno que tiene que hacerlo apoyó o no apoyó la ley le gustó o no le gustó la ley lo tiene que hacer la ley entró en vigor exactamente el uno de enero de dos mil nueve

una vez más el pnv va a tener que hacer

lo primero que debería decirse es que para responder adecuadamente ante las inundaciones y paliar sus efectos

las inundaciones son un fenómeno natural propio de las dinámicas de los ríos que han existido en el pasado que existen y que seguirán existiendo en el futuro obviamente como aquí se ha planteado tendremos que evaluar los daños causados solidarizarnos con los vecinos afectados

lo más diligentemente posible adoptar medidas urgentes habilitar las ayudas económicas que sean posibles y tratar de impulsar las obras que prevengan o reduzcan al menos los daños causados por estas inundaciones todo esto debe hacerse con la máxima coordinación y colaboración entre instituciones limpiar dragar o encauzar los ríos que sean necesarios y sobre todo acometer las obras que sean necesarias para

o evitar que se produzcan catástrofes mayores insisto en que

natural propio de la dinámica de los ríos que han existido en el pasado que existen y que seguirán existiendo en el futuro inmediato por lo tanto en el futuro deberemos gestionar las crecidas fluviales que se seguirán produciendo

contra las inundaciones con medidas inútiles en el caso que nos ocupa después de un mes de lluvias interrumpidas lo raro habría sido que los ríos

el contar con un embalse en cabecera en contra de lo que alguno ha planteado ha permitido en nuestra opinión laminar

o controlar las avenidas que se hubieran producido mucho antes en nuestra opinión las dos únicas alternativas lógicas ante esta realidad

la ordenación del territorio asignando usos del suelo que sean compatibles con la inundación pensando en ese evento natural más o menos repetitivo por otro lado asumir el riesgo y las consecuencias y tratar de paliar estas tanto como sea posible y desde luego

de la administración que no haya dejadez de los representantes políticos y que la administración responda diligentemente cuanto antes de la mejor manera posible los alemanes después de las inundaciones del año dos mil dos optaron por levantar y quitar muros escolleras

que seguir luchando contra el río no había solucionado nada y pasaron a ir de la mano del río y entender sus procesos quizás podamos aprender todos de los alemanes respecto a este asunto en concreto y respeto a las propuestas que se han planteado efectivamente había una iniciativa original del partido popular

porque básicamente estábamos de acuerdo con lo que planteaba el partido popular y porque sinceramente pensábamos que iba a haber un acuerdo mayoritario

se ha llegado a un acuerdo entre todos los partidos políticos en las juntas generales de álava sin embargo no ha podido ser así por razones que no podemos llegar a entender del todo creo que lo más razonable habría sido que hubiera habido un acuerdo mayor

no hubiera sido ni siquiera indispensable para que esta enmienda o parecida hubiera salido adelante este realmente hubiera sido nuestro deseo creo que

básicamente lo fundamental del asunto y por lo tanto insisto no entiendo cómo ustedes no se han puesto de acuerdo en lo fundamental ya digo quizás sea el momento de pedir un receso y que el día san valentín

solventar los líos que tengan yo creo que hay margen suficiente como para que ustedes puedan ponerse de acuerdo al menos en algo y en concreto

esa capacidad de hablar durante unos minutos más para ver si efectivamente podemos o pueden ustedes en este caso que son los que han presentado la iniciativa y las enmiendas llegar

si no es así efectivamente creo que la enmienda firmada por el partido popular con el partido nacionalista vasco recoge lo fundamental que debe hacerse

votaremos a favor de ella respecto a la enmienda del grupo socialista consideramos sin ánimo de incomodar al señor prieto que se va por las ramas hacia proyectos concretos que digamos siguen su curso administrativo ordinario pues no son urgentes o al menos no son más urgentes de lo que eran hace una semana y que a fecha de hoy

a los puntos dos tres y cuatro de la enmienda socialista además el primer punto de la enmienda socialista se refiere a elaborar un informe preliminar de daños que

foral de álava y en cuanto a los puntos cinco seis y siete digamos que lo que ahí se propone ya está recogido en la enmienda transaccional que han firmado el grupo popular

nacionalistas vascos efectivamente nosotros no hemos presentado ninguna enmienda nosotros quisimos realizar alguna aportación posterior nosotros hablamos con la representante del partido popular para plantear la necesidad de que

un registro para el seguimiento de cada uno de los episodios de inundación que ocurren en euskadi colaborando e intercambiando datos con el consorcio de compensación

de las personas y a datos dispersos sino que desde un primer momento

y elaboración de datos creo que podría ser una medida interesante aunque ya digo finalmente no hemos presentado esa enmienda

se podría hacer una valoración acumulativa de los daños y gastos que ocasionan las inundaciones y se podrían comparar también con los gastos en infraestructuras hidráulicas no ha sido recogido exactamente así aunque sí que se recoge en parte al final del punto

la posible realización de un inventario de daños por episodio de inundación

lo que nosotros esperábamos es que ustedes se hubieran puesto de acuerdo pensábamos que se iban a poner de acuerdo en todo caso como no ha sido posible no sé si será posible que esto suceda

firmar o más bien votar la enmienda transaccional que parece

hemos incorporado aunque usted no tenía enmienda que se realice un inventario de daños

probablemente no recoge todo el volumen que usted pretendía de este inventario o registro pero

de alguna manera se recoge su voluntad gracias al grupo

el negociar esta iniciativa no es todo tan fácil como parece y también hemos hablado con el grupo de bildu y también hemos recogido algunas de sus iniciativas señor prieto lamento mucho que mis humildes

no era tan sensible a lo que yo puedo aportar pero mis palabras

en ningún caso a su persona porque en primer lugar porque no conozco nada de su persona solo le conozco como portavoz del grupo socialista por lo tanto difícilmente puedo hablar de usted lo que sí puedo hablar es de lo que usted ha dicho en esta cámara y francamente yo le he pedido que me explique por qué no se han incorporado por qué

propuestas que usted presenta en esta enmienda no estaban en la propuesta que presentaron en juntas

me ha dado la respuesta su voluntad hoy no es hablar aquí de los problemas que las inundaciones causan al sector primario porque no lo ha

esa no es su voluntad su voluntad ha venido a hacer un mitin de lo que usted ha divagado pero no corresponde nada con la iniciativa presentada

efectivamente decía el señor tellería lo que pedimos es que se haga un reglamento porque es lo básico lo fundamental lo que hemos pedido durante cuatro años en esta cámara

como decía el señor tellería les dimos la oportunidad de gobernar han estado en el gobierno tenían una ley para desarrollar no la han desarrollado lo harán otros

con qué parámetros vamos a declarar zona catastrófica hay que hacer el reglamento

tampoco tiene el reglamento y lo único que dice la ley es a solicitud de las administraciones a solicitud

hacer ese marco que le deja la ley no le deja más porque no

por lo tanto lo que hace es llamar la atención del gobierno en ese pequeño campo que le da la ley el artículo ochenta y tres que es lo que ha hecho porque es

me decía usted que han activado tres veces el fondo de catástrofes yo hice una pregunta al gobierno la respuesta tiene fecha de veintiocho de marzo de dos mil doce y pregunté que todos los presupuestos el dos mil nueve el dos mil diez el dos mil once dos mil doce tienen una partida porque así lo dice la ley de fondo de catástrofes y tiene una dotación presupuestaria y yo pregunté qué habían hecho con esa partida en el dos mil nueve dos mil diez y dos mil once en el dos mil nueve

en el dos mil diez se ha imputado en dicha partida una subvención directa a lorra para la gestión

ochocientos ochenta euros en el dos mil once no se ha ejecutado ninguna acción

señor prieto el fondo de catástrofes no está activado no se ha utilizado para lo que se debería utilizar o que es el fundamento de esta partida

hábito que lo han cogido ustedes y lo han practicado con mucha soltura para el tratamiento de purines no sabemos cuál era el fundamento

eso es para lo que han utilizado el fondo de catástrofes y señor

usted no ha hecho la enmienda con voluntad de llegar a acuerdo ha hecho una enmienda para no llegar al acuerdo y por lo tanto es su responsabilidad nosotros hemos hecho la responsabilidad que nos corresponde tanto en la diputación como en esta cámara le hemos pedido reiteradamente que se active

haga el reglamento no ha sido atendida nuestra petición y yo

sí se haga y señor maneiro decía un receso

él sabrá si lo quiere hacer o no yo de verdad que he agotado todas mis posibilidades creo que ayer

hasta bastante tarde el señor prieto desde un momento mostró el no

yo hablo con quien me da opción el que se cierra y no quiere pues sin más

al señor maneiro decirle que estoy de acuerdo con que se haga un receso de alguna forma usted se ha comprometido también a facilitarlo usted no tiene por qué volcarse sobre una enmienda que cree

que el receso lo quiere provocar para que se mejore y para que haya una suma de voluntades en esta cámara me parece bien nosotros aceptamos el receso y esperamos que la señora ocariz y el grupo nacionalista señor tellería

porque aquí no vale lo que se plantea entre pasillos aquí vale lo que se escribe lo que se propone y nosotros hemos planteado y hemos propuesto algunas cosas muy concretas están ahí ya sabe todo el mundo lo que quiere nuestra voluntad de acuerdo es evidente está sobre

que la voluntad de acuerdo de los demás es no ya hacer lo que usted planteaba

la moción aprobada por unanimidad en las juntas generales decía las juntas generales instan al gobierno vasco a que declare con carácter urgente zona catastrófica

también un asesoramiento similar al que pueda tener usted en esta materia

decía a que declare con carácter urgente zona catastrófica bien todos quieren declarar con carácter urgente zona catastrófica hasta que llegamos enmienda transaccional y lo que plantean los tres grupos es a que analice con urgencia la solicitud de la diputación foral de álava y en su caso

rebajar la unanimidad que había en

si ustedes están de acuerdo a pedir a instar políticamente como se ha hecho en las juntas generales por todos los grupos presentes

nosotros nos sumamos a una enmienda transaccional si además tenemos que plantear en vez de la urgencia de algunas obras

la parte urgente ningún problema fijamos algunas de las obras y comprometemos a las distintas instituciones ayuntamientos gobiernos diputación etcétera

o se quiere hacer como tantas y tantas veces ha ocurrido en este parlamento eso que llamamos

una pnl para pasar el rato una pnl para no concretar nada y yo creo que estamos en condiciones de poder concretar unas cuantas cosas

el gobierno anterior el gobierno socialista en relación a catástrofes

repase no he dicho ninguna he dicho que sí se actuó y efectivamente se actuó y vaya por ejemplo usted a las inundaciones de gipuzkoa

en ayuda al respecto pero me ha sorprendido mucho una reflexión que ha hecho el señor tellería o más que una reflexión una afirmación

yo no creo que el reglamento de la ley sea el centro del debate el reglamento de la ley será una parte importante a la hora de acudir en ayuda

para nosotros es solo una parte emergente o de emergencia

del debate que es atender a las inundaciones el problema de fondo es que las inundaciones no se vuelvan a suceder pero usted que ha echado mucha mano de la ironía

ha tapado algunas cosas que son un profundo despiste la ley a la que usted se refiere el reglamento de la ley al que usted se refiere es una ley aprobada

del año dos mil ocho en esta cámara y es una ley que se puso en vigor el uno de enero del dos mil nueve cuando ustedes estaban gobernando

no hubo toma de posesión del gobierno socialista luego podían haber dejado la ley y el reglamento luego podrán decir que durante el gobierno socialista

se desarrolló el reglamento y es cierto que no se desarrolló el reglamento ahora lo que también tendrán que asumir es que ustedes cuando hicieron la ley

la responsabilidad en todo caso será compartida y no como usted ha venido a plantear aquí que como no lo hizo el gobierno anterior una vez más le tocará

a este gobierno hacerlo este gobierno lo tuvo que hacer y no lo hizo y por lo tanto ese es el fondo del asunto yo planteo propongo que haya ese receso que usted haga señor maneiro de maestro de ceremonia y que podamos llegar a un acuerdo

el centro del debate es si se declara o no

pero el centro del debate para declarar zona catastrófica es el reglamento de aplicación

si usted pone como condición previa no

para qué vamos a hacer un receso hemos acordado mayoritariamente en este parlamento bajar no bajar lo que se decidió poner en razonabilidad lo que se decidió y lo que

por unanimidad solicitaron a juntas generales al gobierno vasco la declaración quien tiene que solicitar la declaración de zona catastrófica es la diputación que ya lo hizo

pero probablemente está yéndose de su ámbito de decisión que le pidan a la diputación que lo solicita al gobierno eso es lo razonable a partir de ahí nos hemos dado cuenta varios grupos de esta cámara menos usted que tenemos que poner orden en las cosas aplicar la ley

desde la aprobación de la ley ustedes estuvieron cuarenta y dos meses y el grupo nacionalista el partido nacionalista tiene un principio que es que cuando se está acabando la legislatura y se estaba acabando la legislatura en febrero no tomamos decisiones que vinculen al siguiente que venga a gobernar y no lo hicimos

a nosotros nos hubiese tocado uno y a ustedes treinta y nueve y creo que han hecho dos o tres tengo que contabilizar a este gobierno le va a tocar

es como si una ley de trafico inicial dijera quedara penado ir a mucha velocidad

que la multa es de tanto si no hay reglamento

qué significa miramos la ley y no significa nada

y el fondo de catástrofes exige un reglamento para decir cuánto se da a quién se da cómo se da cuándo se declara zona catastrófica podemos declararla no pasa nada

eso sí que es pájaros y flores muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

de manera muy breve únicamente para decir que creo que este parlamento y en general todos los parlamentos no están solo para ganar o perder votaciones por un voto o

de ampliar acuerdos de sumar voluntades y sobre todo de dar soluciones de ahí nuestra predisposición a votar de manera favorable la iniciativa original y después esta enmienda transaccional que nos parece razonable

todos los grupos o la mayoría de los grupos votarán a favor de esta enmienda transaccional y sería interesante que todos los grupos finalmente se sumen al consenso y me parece

únicamente queda usted por sumarse a este consenso y yo le pido que reflexione en los pocos segundos que pueden quedar hasta que lleguemos a la votación para que efectivamente

en temas como el que se trata hoy aquí no debería haber ningún tipo de problemas para apoyar ya digo de manera mayoritaria o de manera absoluta transaccionales que creo que plantean soluciones y creo que compartimos todos los aquí presentes por lo tanto
señor prieto súmase usted al consenso gracias eskerrik asko maneiro jauna

beste merituekin compartimos aquellas manifestaciones del consejero bengoa del exconsejero de sanidad del gobierno vasco cuando decía

y creo que aquí a todos nos gustaría que fuese una solución más que un problema coincidimos con el consejero en el diagnóstico de la situación pero no en la solución propuesta por parte del ejecutivo socialista

en varias iniciativas entre ellas en una interpelación que este grupo le formuló al consejero anterior hubo posibilidad de acabar con las injusticias y

en esta cuestión pero una vez más señores socialistas nos defraudaron y defraudaron las esperanzas de miles de vascos

ya lo manifestamos con absoluto contundencia en su momento y lo volvemos a reiterar ahora al gobierno socialista le faltó

a la hora de modificar los excesos de las políticas lingüísticas de los gobiernos nacionalistas anteriores es un hecho constatado que el euskera se ha valorado de forma desmesurada tanto en la asignación de los correspondientes perfiles lingüísticos

y la formación es un hecho que el conocimiento del euskera se ha convertido

es un hecho que el sistema arrastra claras disfunciones e incoherencias que no se puede obviar y que hay que corregir y subsanar paso a comentar alguna de ellas el euskera no era un plus

de que alguien que obtenía un lugar treinta y cinco en las listas de contratación y que luego por el conocimiento y la valoración del euskera bajaba a ocupar automáticamente el ciento treinta y cinco había plazas con preceptividad que no se cubrían

con preceptividad vencida y que no había conseguido acreditar el nivel requerido

acceden a mejores puestos puestos en las capitales en las ciudades importantes precisamente en aquellos lugares en donde la demanda del uso del euskera es menor

plazas con preceptividad que están sin cubrir

y que otros han tomado la decisión de irse ante la falta de oportunidades euskara eskatzea eta hainbeste baloratzea

a la vez creo que corregir excesos y reparar injusticias es absolutamente compatible con el objetivo de avanzar

progresiva del euskera en los diferentes ámbitos de la administración pero siempre claro está sin vulnerar otros derechos como es el derecho de acceso en condiciones de igualdad a un puesto en la administración pública consideramos que la enmienda acordada entre el pnv

no da soluciones a la cuestión de fondo de la excesiva exigencia del euskera en relación con otros méritos

por otra parte ustedes toman como base el decreto sesenta y siete barra dos mil tres de dieciocho

que es lo que nosotros desde hace algún tiempo queremos que se derogue

un punto de inflexión en este punto con los votos del partido socialista upyd y partido popular el veintiséis de octubre de dos mil nueve que señalaba lo siguiente el parlamento vasco insta al departamento de sanidad y consumo del gobierno vasco

de forma que busque el equilibrio con la puntuación correspondiente a los méritos profesionales

insta al departamento de sanidad y consumo a adoptar cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para que se garantice el principio de acceso en condiciones de igualdad a la función pública

entre el partido socialista upyd y partido popular posteriormente se llega al once de febrero de dos mil diez a otro acuerdo en el parlamento vasco en donde se señala lo siguiente se insta al gobierno vasco a

cuantas medidas sean necesarias para que se garantice el principio de acceso en condiciones de igualdad a la función pública realizar una valoración adecuada del conocimiento del euskera como mérito en las futuras opes de forma que se busque el equilibrio con la puntuación correspondiente a los meritos profesionales

de las rpt de la administración pública vasca en función de las necesidades del servicio

y de la necesidad de garantizar el derecho a relacionarse con la administración

la enmienda que hemos presentado a esta iniciativa por parte del grupo popular es la iniciativa que se aprobó en este debate comprende este texto junto con lo establecido en el estatuto de autonomía del país vasco

de garantizar el uso de las dos lenguas oficiales arbitrando los medios y medidas necesarios para su conocimiento teniendo en cuanta la diversidad socio lingüística en el país vasco ustedes en su enmienda de transacción

este párrafo del estatuto que yo creo que es el punto de encuentro fundamental entre todos los grupos o debería de serlo en esta cámara por lo tanto no ha habido

del estatuto que es nuestro primer punto de la enmienda presentada estas como

que se desarrolle en el ámbito de nuestra comunidad con el fin como decía anteriormente de que no se produzcan o no se reproduzcan excesos y abusos que conocemos

y discriminatorias esta es la posición que hemos defendido y que vamos a seguir defendiendo en esta cámara pero a tenor del resultado en este debate parece ser

nuestra enmienda y no votaremos a favor de la enmienda de transacción acordada

presidenta eh bildu nos propone en su iniciativa establecer movilizar recursos nuevos recursos más recursos para

del euskera en nuestra opinión esto no es en absoluto prioritario sino todo lo contrario no podemos olvidar la situación de crisis económica en la que nos encontramos la situación de estrecheces presupuestarias en la que nos encontramos por lo tanto da la sensación de que para el fomento del euskera siempre hay recursos

y por lo tanto votaremos en contra de la transaccional que ustedes han firmado en este punto en concreto no llamaremos al consenso sino que defenderemos

nuestra enmienda que por otro lado creo que es bastante clara yo quería hacerles algunas

para qué al menos reflexionen en los próximos días o semanas cuánto dinero se ha gastado en euskadi para el fomento del euskera en las últimas décadas qué resultados se han obtenido qué

de prestar por ello creo que sería interesante al menos reflexionar sobre la materia quizás la representante de eh bildu me pueda dar algún dato por los datos que nosotros tenemos en los últimos cuatro años en lo que es el departamento de sanidad

o para la euskaldunización se ha gastado nada más y nada menos que

habrá que ver efectivamente qué es lo que se ha gastado en otros departamentos y no solamente en los últimos cuatro años sino en todas las décadas anteriores creo que sería un buen dato que todos deberíamos tener para reflexionar sobre la materia sin embargo todo es insuficiente siempre para el fomento del uso del euskera y si no ya esta aquí eh bildu para recordarnos que tenemos que

nuevos recursos para impulsar más normalización

de imposición lingüística nosotros defendemos políticas para el fomento del euskera obviamente otra cosa es que los recursos que se destinan para ello tengan que ser ilimitados incluso en momentos como decía antes de crisis económica estrecheces presupuestarias y otra cosa es que no seamos capaces de analizar seriamente los resultados que estas políticas muchas de imposición

han tenido creo que sería interesante reflexionar cuánto hemos gastado

y qué hemos dejado de hacer para fomentar más más y más el uso del euskera nosotros pensamos que esto

no puede ser aunque sea en solitario en fin ya digo millónes millónes y millónes de euros

del euskera resultados ciertamente limitados como ustedes podrán conocer por algunas encuestas que se vienen realizando y además de todo ello políticas impositivas políticas de imposición lingüística que

ni el partido popular conviene recordarlo quisieron cambiar durante los últimos tres años y medio ciertamente fue una oportunidad perdida para acabar con esas políticas de imposición pero sin embargo y a los hechos me remito

el partido socialista no quiso y el partido popular no movió un dedo para acabar con estas políticas de imposición la realidad de los hechos por lo tanto no está mal que al menos un parlamentario de entre setenta y cinco ponga encima de la mesa estos hechos y estas realidades ya que todos los demás partidos

prefieren mirar para otro lado y es por esto que nosotros hemos presentado esa enmienda que ustedes conocen donde nos centramos en lo que en nuestra opinión

la representante de eh bildu en un tono amable

poco a poco con tranquilidad en el fomento y uso del euskera porque efectivamente

su forma de expresarse y algunos de los parlamentarios aquí presentes se expresan en un tono amable pero

las prácticas que bildu por ejemplo sin ir más lejos está aplicando allí donde nos desgobierna prácticas que yo definía la semana pasada como prácticas

impidiendo incluso que determinadas empresas no puedan acceder

o con tranquilidad es justo todo lo contrario ustedes proponen y defienden políticas de imposición lingüística y por lo tanto nosotros vamos a decir que no

y a todas esas políticas y planteamientos que han venido realizando en los últimos tiempos y que van a seguir poniendo encima de la mesa también en este al parecer el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialista se suman a ese consenso y obvian otro tipo de debates nosotros hemos querido centrar

nosotros lo que queremos es que este parlamento vasco en momento de crisis en momento de estrecheces presupuestarias inste al gobierno vasco a que garantice a través del servicio vasco de salud una asistencia sanitaria de calidad universal y gratuita

en materia sanitaria y proponemos que este parlamento vasco inste al gobierno vasco a priorizar el gasto sanitario en los aspectos de prevención de la salud y asistenciales vivimos momentos de crisis económica y por lo tanto priorizar los recursos son escasos y para nosotros lo prioritario en este momento es garantizar el derecho a la salud después de décadas destinando millónes de euros al fomento del euskera y aplicando políticas de imposición lingüística creo que no está mal que al menos un parlamentario de entre setenta y cinco que también es importante de hecho es lo prioritario y es lo fundamental que lo importante y lo fundamental es garantizar una asistencia sanitaria de calidad

y que el gobierno vasco debe priorizar en estos momentos de crisis el gasto sanitario en los aspectos de prevención de la salud y asistenciales por lo tanto lo prioritario hoy es acabar con las políticas de imposición lingüística y garantizar la mejor sanidad posible nosotros nos vamos a dedicar a ello

qué es lo que nosotros entendemos que es prioritario garantizar el derecho a la salud y acabar con las políticas de imposición lingüística que por otro lado han tenido unos resultados ciertamente

surgió del consenso político entre diferentes poco a poco

y sin parar aunque a unos les parezca mucho y a otros poco

un consenso político que tiene por objeto llegar a una sociedad que garantice el bilingüismo efectivo de la ciudadanía

horretan decía la señora laura garrido ha sacado usted un tema que quizá tenía ganas de sacarlo quizá estaba presente en su enmienda pero no era el objeto del debate de hoy

ofertas públicas de empleo y yo debo decirle que las ofertas públicas de empleo que se han hecho en la pasada legislatura eran por primera vez abiertas a toda la ciudadanía y era por una razón muy sencilla y se la voy a explicar que porque va vinculada

tradicionalmente se solía elaborar un temario con un número de preguntas cerrado y eran esas preguntas las que memorizaban los opositores

aprendérselas de memoria y por lo tanto la parte de conocimientos pasaba a un segundo plano y por lo tanto lo que realmente dotaba de valor a la hora de acceder a una plaza o entrar en la escala de puntuación era el conocimiento accesorio de otras cuestiones de idioma los cursos los masters sin embargo nosotros cambiamos el sistema por qué cambiamos el sistema porque creíamos que las opes tenían que ser abiertas a toda la ciudadanía

indudablemente sino a cualquier ciudadano o ciudadana que quisiera pasar a formar parte de la administración

en documentación y en respuestas que se ha dado a este parlamento en la legislatura pasada

yo creo que vienen tiempos ahora y vamos a tener ocasión de

enmienda transaccional cuando el departamento de sanidad traiga las evaluaciones de los planes cuando elabore el nuevo plan y se pueda debatir en la cámara sino que también vamos a poder ver al departamento de cultura y de política lingüística

la misma valoración no tiene que tener el mismo perfil lingüístico ni los exámenes tiene que ser iguales

documentos o estos son documentos tipo que solo tienen que ser rellenados parcialmente que una persona que realiza labores

en la administración general por lo tanto también tendremos ocasión de debatir de hacer aportaciones y esperemos que el gobierno

la enmienda transaccional de hoy recoge cuestiones que son consolidar los pasos dados

y hay que garantizar a los ciudadanos con la realidad señora la realidad es la que es pero hay que seguir avanzando en garantizar a los ciudadanos que puedan acceder a las ventanillas a la relación directa con la administración en euskera y en castellano es la obligación de la administración vasca hacerlo

señora mendia pues sí denunciamos y lo volvemos a reiterar la falta de valentía de coraje de determinación quizás por ciertos complejos

tuvo la oportunidad tuvo el amparo de dos acuerdos en esta cámara que le posibilitaban al señor consejero el señor bengoa

de rumbo la política lingüística que estos señores nacionalistas habían llevado a cabo durante treinta años esa política

y que fue a marchas forzadas y vulnerando claramente

de acceso en condiciones de igualdad a la función pública usted me habla de que se cambió

una forma de acceder el examen de oposición de ir de un temario de preguntas cerradas que obviamente todo el mundo se las aprendía de memoria y todo el mundo

pero es que no fue suficiente señora mendia porque viendo los datos en la fase de méritos

de ochenta y siete puntos la formación y la experiencia eran setenta

con ustedes en méritos noventa y ocho puntos formación y experiencia ochenta y el euskera dieciocho es decir

con ustedes bajó apenas un punto un dieciocho coma cuatro por ciento cuando los señores nacionalistas fue un diecinueve coma cinco por ciento es decir un punto bajó

las bases de las convocatorias correspondientes por eso vuelvo a reiterar al ejecutivo socialista anterior

para cambiar una política lingüística y digo que tenía el soporte de dos acuerdos parlamentarios que le decían lo que le decían que tenía que haber una presencia equilibrada del euskera en relación con otros méritos

de igualdad en el acceso a la función pública una presencia equilibrada con otros méritos y respetar también la realidad sociolingüística y la demanda

yo he dicho que hay absolutas paradojas tenemos aquí teniendo una puntuación buena puntuación porque ha acreditado un determinado nivel de euskera

en los que la demanda del euskera pues sí hay demanda de atención en euskera en muchos pueblos

destinos por lo tanto son situaciones que hay que corregir yo como decía el consejero anterior sentido común pero parece que ustedes el sentido común pues no lo tuvieron eta

cuando estuvo en este parlamento que estuvo mucho tiempo y cuando estuvo de consejera en el gobierno vasco

estaba en otros menesteres pero tenemos aquí parlamentarios del grupo popular de una dilatada trayectoria en este parlamento que desde luego no recuerdan a la señora

del dinero que gastaba el gobierno vasco en políticas del euskera ni oyó nunca decir nada acerca de la valoración del euskera en las opes ni en nada que se le parezca quizá será pues estaba también en otras cosas

decir a la señora consejera el dinero que se gastaban estos señores nacionalistas en políticas del euskera ya le digo que sería porque estaba en el gobierno vasco o porque también votó a favor

de esas políticas lingüísticas por parte de los señores nacionalistas por lo tanto señor maneiro

vamos a traer aquí la trayectoria política de cada uno y si hace falta la de la señora

que upyd había formado parte del gobierno vasco no recordaba que upyd hubiera tenido consejeros

es el reflejo de la impotencia del partido popular para hacer frente

a la coherencia de upyd en este asunto y en tantos otros como a continuación veremos como en el siguiente punto veremos y en algún otro

nuestra coherencia y por lo tanto tienen que andar detrás nuestro para ver si consiguen seguir

somos coherentes defendemos esto desde el principio y lo seguiremos defendiendo ustedes estuvieron tres años y medio mirando a las musarañas no hicieron nada

de los planteamientos que hacía upyd y ahora tres años y medio después pretenden cargar todas las culpas

socialista no hombre no ustedes también tuvieron responsabilidad ustedes podían haber hecho valer sus escaños para tratar de

a mirar a las musarañas yo creo que hay que trabajar más y mejor y por lo tanto les animo a eso ciertamente ya ha pasado ese tiempo han dejado pasar una oportunidad nosotros en cualquier caso seguiremos manteniendo nuestra coherencia

hablaba de respeto sabemos qué entiende por respeto ehb impulsar o defender políticas lingüísticas en todos los ordenes de la sociedad en la educación en la sanidad

innecesarios para realizar perfectamente el trabajo que tienen encomendado eso para ustedes es respeto hacer la vida imposible a miles de ciudadanos

cuando resulta que no era necesario saber euskera para hacer perfectamente su trabajo expulsar de euskadi a miles de ciudadanos vascos por esta cuestión es para ustedes respeto sí sí expulsados porque no tenían la capacidad suficiente para acceder a determinados puestos y les exigía saber euskera no conocen ustedes esa realidad

que se han encontrado en esta situación porque es un hecho absolutamente real gente que ha tenido que irse

imposible al exigirle conocimientos lingüísticos que no requerían en ningún caso para hacer perfectamente su trabajo personas cualificadas y perfectamente preparadas

y que ustedes vienen aquí a seguir defendiendo presionar a padres y madres para que matriculen a sus hijos en determinado modelo lingüístico para ustedes eso es respeto aplicar o proponer multas lingüísticas para ustedes eso es respeto impedir que empresas puedan acceder

para ustedes eso es respeto pretender reconvertir

respeto negarse a dar avisos de emergencia a los ciudadanos en castellano como acabamos de ver por parte de la diputación foral de gipuzkoa para ustedes eso es

recursos y no analizar los resultados obtenidos para ustedes eso es respeto en fin que ustedes hablen de respeto solamente en este asunto lingüístico clama al cielo para fomentar el uso del euskera

eso es lo que nosotros defendemos y obviamente el nacionalismo en su conjunto no es muy amigo de la libertad y ustedes que representan lo que representan pues lógicamente

bitartekoak aipatu izan dituzu esan duzu que los recursos no pueden ser ilimitados

zehatzak eta aurrekontuetan sartutakoak direla los recursos destinados son limitados concretos y presupuestados oraingo

sociedad española de medicina familiar y comunitariak egindako ikerketa baten arabera un cincuenta y uno por ciento de estudiantes de medicina

entre los destinos preferidos por los encuestados reino unido estados unidos canadá y portugal eta nire galdera

este parlamento decidía por práctica unanimidad

el ciclo de la violencia terrorista y asentar sobre bases democráticas la convivencia en este país dije entonces en mi intervención del pasado treinta de marzo

porque no iba a acabar en esa legislatura y añadía también que estábamos dispuestos a trabajar en serio gestionando con la unidad de todos los partidos democráticos

tras la derrota de eta por las instituciones democráticas y la presión de la sociedad vasca

basada en el relato que los demócratas compartimos el relato de una paz con memoria con libertades

con respaldo a las instituciones y a las leyes y con reconocimiento a las víctimas del terrorismo en esa dirección ha trabajado la ponencia durante los meses anteriores

precisamente el relato que se plasmó en el acuerdo de julio del pasado año entre los grupos parlamentarios un acuerdo que constituye un suelo ético y político irrenunciable

un acuerdo por cierto que contó con el respaldo de setenta y dos de los setenta y cinco parlamentarios del parlamento vasco y un acuerdo que entendemos deberá ser igualmente asumido

y deberán lógicamente incorporarse al trabajo que los demás hemos realizado y deberán hacerlo con sinceridad y entiendo que con la humildad necesaria reconociendo

de euskadi no ha empezado con ellos ni con su reconversión a las vías legales y democráticas porque no aceptaremos que quienes se incorporan a la democracia pretendan marcar el paso

como no aceptaremos tampoco que quienes hasta ayer defendían a eta o no la condenaban traten de eludir el daño inmenso que el terrorismo etarra ha venido causando a este país con la coartada de otras violaciones de los derechos humanos violaciones por cierto que los socialistas vascos hemos denunciado y de manera activa y sobre las cuales además hemos desarrollado políticas concretas en nuestra etapa de gobierno como es sobradamente conocido pero que no pueden ser nunca consideradas como coartadas para justificar

en un contexto de violencias y de bandos enfrentados y nos parece por eso una tomadura de pelo que euskal herria bildu nos diga ahora que hay que establecer un nuevo consenso

que existe ahora en el parlamento vasco porque estamos hablando de algo básico y algo básico es la defensa de la convivencia de las libertades de la democracia que desde luego no puede quedar al albur de las mayorías o de las minorías parlamentarias o políticas

y en cualquier caso si quieren ustedes que hablemos de correlación de fuerzas habrá que hablar de una mayoría de cincuenta y cuatro parlamentarios y parlamentarias de esta cámara actualmente

y habrá que hablar de una mayoría parlamentaria que está diciendo que la memoria constituye una herramienta esencial

ética y política del terrorismo parlamentarios y parlamentarias que defienden abiertamente un suelo ético y político

que reclaman un consenso diferente ilegítimo

y hecho a su medida la misma mayoría parlamentaria que todavía tiene que denunciar por desgracia presiones y amenazas contra quienes discrepan de políticas de bildu allí donde gobiernan como ocurre en determinadas poblaciones de gipuzkoa

una mayoría empeñada en defender que la acción política y el debate político se lleven a cabo respetando escrupulosamente los derechos de los demás y las reglas de juego del sistema de libertades y los partidos democráticos

donde creo que nos jugamos el ser o no ser de este país no debiéramos de estar dispuestos a rebajar nuestras exigencias y criterios al menos los socialistas

porque son ustedes señoras y señores de bildu quienes tienen que seguir dando pasos y reconozco que han dado muchos hacia la democracia y no los partidos democráticos los que deben de abandonar sus principios

y eso creo que hay que dejarlo claro desde el principio tenemos en cualquier caso

un cauce político para abordar la euskadi en paz que queremos construir tras el fin del terrorismo de eta y este cauce es esta ponencia

que creo que esta demostrando su eficacia y se capacidad para llegar a acuerdos

básico que haya que consolidar y en el que debemos profundizar para que lo que estamos haciendo no tenga marcha atrás

una larga travesía para asentar la convivencia en un país tan marcado todavía por la cultura de la violencia y la coacción y por odios y enfrentamientos que la violencia ha ido sedimentando a lo largo de décadas para consolidar ese nuevo tiempo

en el que el fin del terrorismo sea una realidad con todos los retos que nos plantea y entre ellos

y la reinserción de presos y huidos que la acción de eta ha ido dejando por el camino terminar con restos de actitudes totalitarias e intolerantes

aún se ven en algunos ámbitos de la sociedad vasca e instaurar un sistema de concordia entre la ciudadanía asumiendo los valores de la democracia de la legalidad democrática

que ansía la sociedad vasca pero que distan todavía de haberse conseguido porque es verdad que con el acuerdo y el esfuerzo de partidos instituciones y ciudadanía

pero es verdad también que todavía nos resentimos de la herencia letal

y todavía hoy se utiliza el acoso y la amenaza contra quien piensa de manera diferente como instrumento de acción política y hay aún determinados sectores de nuestra sociedad que aprovechan cualquier acontecimiento público de relieve como por ejemplo el último partido amistoso entre las selecciones de euskadi y de bolivia para recordarnos que la violencia no ha acabado aún de despejarse en este país y todavía hoy tenemos una fuerza política ustedes que lejos de condenar

y lanza las acusaciones hacia otros porque todavía en lugar de defender la policía vasca

y de todo esto también hay que hablar en la presente legislatura también de esas actitudes y hay que buscar soluciones

con situaciones que como esta son herencias indeseables del pasado y tenemos que hacerlo sin olvidar desde luego pero con ánimo integrador hablando entre todos en el marco de una ponencia en la que tenemos que estar todos también el partido popular y también el señor maneiro y también ustedes

los socialistas queremos que estén en la ponencia porque ya no tienen excusas para no estar y queremos que nos aporten sus razones por supuesto y sus propuestas y su análisis que escucharemos atentamente pero ustedes nos tendrán que oír también a nosotros a los socialistas

y cómo lo vemos y para eso estaremos en la ponencia si deciden participar nos oirán y les oiremos a ustedes y en el debate monográfico que ustedes han planteado en esta cámara sobre pacificación

y también expondremos nuestras razones porque no estamos desde luego dispuestos a comulgar con ruedas de molino ni a extender una especie de manto de olvido

tendrán que oír que el terrorismo que hemos sufrido durante décadas no ha sido como parecen pretender ustedes la expresión de un enfrentamiento entre partes ha sido consecuencia de un empeño de una organización terrorista de acabar con el pluralismo de la sociedad vasca y son visiones distintas

ha sido consecuencia también de la obstinación de una organización terrorista alzada en armas contra la democracia y las instituciones representativas de este país

que durante decenas de años se propuso reventar con bombas la voluntad que los ciudadanos de euskadi expresaban en las urnas y eso no se puede escamotear a este país

como tantas veces se recomienda con una especie de expediente cómodo para no tener que abordar los temas que molestan

entiendo que igual que ustedes pero la queremos basada en la memoria la verdad y la justicia que este país sí merece y especialmente la parte de este país que más ha sufrido el acoso de la violencia de eta como son las víctimas del terrorismo y no nos olvidamos

y nuestra capacidad de diálogo y nuestra voluntad de acuerdo para hacer posible ese entendimiento básico y necesario entre las fuerzas políticas

el fin de la violencia y una euskadi en paz y convivencia por la que tanto hemos luchado

los representantes de esta cámara estemos absolutamente comprometidos muchas gracias eskerrik asko pastor jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda mistoa